gizarte osoari on egiten dion eskubidea hoy es también un día de celebración por los avances conseguidos

en los escaños de esta misma cámara es un reflejo del camino recorrido la aprobación de la ley para la igualdad de mujeres y hombres en dos mil cinco que tanto ha contribuido a este equilibrio

es asimismo día de convocar a la opinión pública día de reivindicación porque a pesar de los profundos avances logrados el camino por recorrer para la efectiva igualdad de las mujeres y de los hombres

la igualdad real y efectiva sigue siendo un reto baina horretaz gain

la principal preocupación el mayor problema de la ciudadanía vasca es sin ningún género de dudas la crisis económica y especialmente su consecuencia

la destrucción y la falta de empleo y eso es lo que llevó al grupo parlamentario socialista ha anunciar

que una de sus primeras iniciativas en esta legislatura iba a ser solicitar la celebración de un pleno monográfico para debatir y proponer medidas de crecimiento económico y de lucha contra el paro es decir

asuma su obligación de ser un instrumento útil para la sociedad a la que representa y dar respuesta a sus verdaderos problemas y es que hoy tenemos ciento setenta y ocho mil razones para celebrar este pleno

su situación y que necesitan y demandan respuestas y resultados la economía no va bien

decrece nuestro índice de producción industrial tiene un descenso acumulado del siete coma siete por ciento

y tenemos que ser capaces de enfrentarnos a esta situación

ya sabemos que no hay varitas mágicas que incluso algunas cosas o muchas no dependen solo de nosotros pero hay que adoptar decisiones

no podemos limitarnos a ser notarios de dificultades ni de realidades injustas la política los políticos este parlamento y el gobierno en primer lugar

no puede decir qué mal está todo y no hacer nada es agente activo y tiene que salir de la inacción en la que está sumido y tiene que gobernar

del propio lehendakari no se resuelven describiendo calamidades anunciando sacrificios sin más esperando a que se solucionen por sí mismas se resuelven con planes con proyectos con medidas que vayan a la raíz del problema y para eso estamos hoy aquí desde luego para eso estamos los socialistas lo hicimos actuando y lo hacemos ahora en la oposición arrimando el hombro y proponiendo acciones que para nosotros son imprescindibles y para acertar

en el diagnóstico para saber de verdad a qué nos enfrentamos porque todos reconocemos incluso así lo expresamos que vivimos en medio de una crisis que no es solo

que diferentes crisis se solapan se retroalimentan hasta generar una situación francamente preocupante que afecta a todo y a todos y a todas crisis económica crisis política crisis institucional crisis social crisis de valores crisis que no sé si tienen

pero que desde luego están teniendo unas consecuencias demoledoras para la ciudadanía para el bienestar general para la cohesión social e incluso

sistema democrático hoy no toca ni podríamos hablar de todo pero hay asuntos relacionados con la economía que eso sí toca hoy que están acelerando y aumentando estas situaciones de crisis y de eso sí que tenemos que hablar aquí porque me niego a admitir ese reduccionismo lineal

igual a menor actividad de las empresas menor actividad menor producción menor producción pérdida de empleo y por lo tanto menor riqueza y ya está no hay más porque es verdad que esto es así

hay mucho más hay muchas más cosas que están pasando y que están provocando impactos muy negativos

la cohesión social y esa fractura de la cohesión social es para mí lo más preocupante de la situación que estamos viviendo la fractura social

todo lo que hemos ido construyendo en los últimos tiempos y lo explico primero la diferencia cada vez mayor de salarios

que a la mayor precariedad laboral ha añadido unos sueldos sustancialmente menores de los que tradicionalmente han venido percibiendo los trabajadores y trabajadoras tanto que hoy para mucha gente

se consideraba de manera peyorativa ser mileurista se considera casi un lujo

se ha producido un incremento irracional de los salarios de los directivos y de los altos puestos de las empresas de todo tipo multiplicando la diferencia entre los salarios de los niveles bajos y los de los altos a unas cotas que se desconocían en europa

solo el año pasado el dos mil doce esta diferencia aumentó en más de un cuatro por ciento en nuestro país

de la crisis la diferencia entre el salario de los directivos y de los trabajadores aumentó un cuatro por ciento hay algo que justifique esto

y los trabajadores menos como para justificar la subida de unos salarios y la bajada de otros no esto es simplemente

inaceptable y además hoy día internacional de la mujer tenemos que constatar y denunciar que se sigue soportando una desigualdad

la máxima de a igual trabajo igual salario hasta un dieciséis por ciento

injusta un quebranto arbitrario de la igualdad entre personas y esto que estoy diciendo aquí

para muchos expertos incluso internacionales

precisamente este aumento de la desigualdad es considerado como la mayor amenaza

incluso como la mayor amenaza para nuestros propios sistemas democráticos porque

puede llevar a la quiebra de los consensos básicos sobre los que se sostienen estos sistemas por lo tanto en esto también debemos intervenir esto no es ajeno a lo público a nuestra labor política porque como digo está en juego

político y democrático en el que queremos vivir y tenemos que poner límites y frenos a ese aumento de la desigualdad también en los salarios segundo fenómeno la desregulación de las entidades

una carrera alocada de la economía especulativa que es verdad que ha procurado enormes beneficios a sus directivos y a algunos grupos de presión pero que ha arruinado a economías enterosy esto no puede seguir así todos estos movimientos especulativos tienen que tener límites y controles tenemos desde la política que poner límites y controles para impedir que campen a sus anchas y sigan jugando con el bienestar y el futuro de millónes de personas que están siendo arrojadas a la marginación

tercero la desregularización del mercado laboral porque esto es lo que ha sucedido las diferentes reformas laborales que tenían como objetivo teórico

regular mejor las relaciones laborales lo que han hecho de verdad es dejar indefensos a los trabajadores y a las trabajadoras dando de paso

a los sindicatos algunos nos lo venden como la octava maravilla gracias a su reforma laboral este país está en mejores condiciones para salir de la crisis incluso vienen de fuera

no sé cuántos puntos nuestra competitividad ya pero la hemos aumentado

a costa de precarizar las condiciones laborales a costa de abaratar los despidos de reducir salarios de recortar derechos bueno pues ese no es

con china en sueldos ni en condiciones laborales indignas yo quiero competir en innovación en investigación en aportación tecnológica en valor añadido

mientras que lo que hay que hacer con la reforma laboral que nos precariza es simplemente derogarla cuarto fenómeno una bajada continuada de la presión fiscal

de la presión fiscal sino que además la mayor parte de esa presión se ha trasladado a las rentas de trabajo y a los impuestos indirectos lo que manifiesta una evidente injusticia en el reparto de las cargas en euskadi tenemos una presión mucho más baja

que sería escandaloso seis puntos menos que alemania diez puntos menos que francia y diez puntos son

de euros y mientras que la presión fiscal ha bajado en euskadi entre tres y cuatro puntos

resulta que ha aumentado el gasto fiscal y el gasto fiscal es la forma suave que se han abierto vericuetos legales para que algunos paguen menos de lo que les corresponde esto no puede ser porque esto lo único que provoca es que tengamos

a nuestros problemas y para poner en marcha las medidas que necesitamos para solucionarlos por lo tanto hay que dar un giro de ciento ochenta grados a esta tendencia que nos

para dotar las decisiones que necesitamos para combatir la crisis y quinto y por último para no ser muy prolijo la total globalización

una globalización que no está teniendo las mismas facilidades y los mismos efectos en todos los ámbitos los capitales se han convertido en viajeros sin control

más fronteras y como decía todo esto está construyendo una sociedad mucho más injusta con mayores diferencias en su seno

es decir estos son algunos de los problemas que están

nuestro modelo social esto es lo que está desmontando también nuestro modelo del estado del bienestar y por lo tanto estos son algunos de los problemas a los que tenemos que dar respuesta

las diferencias porque no se trata de poner en marcha

a una situación compleja se trata de definir apostar y construir nuestro propio modelo económico y social el problema de la política de verdad

en cómo pensamos unos u otros que debe hacerse el reparto de la riqueza y en eso están aunque alguno se niegue a reconocerlo

porque hay un modelo que desde la derecha neoliberal y con la excusa del control del déficit está desmontando y desmantelando nuestros derechos nuestros servicios públicos nuestras políticas de protección social

lo público a su mínima expresión que privatiza servicios básicos

donde debiera haber rentabilidades sociales y que da libertad total

para que pueda jugar con todos nosotros y nosotras tanto que ha llegado en europa a quitar gobiernos democráticamente elegidos para sustituirlos por tecnócratas a su servicio

absolutamente terrible para cualquier demócrata pero es que además este es un modelo que se nos lleva imponiendo

austeridad y recortes y que lejos de resolver ninguno de nuestros problemas los ha agravado hoy estamos peor que hace cuatro o cinco años por lo tanto por muchos cuentos que nos quieran contar este además es un modelo fracasado

para resolver nuestros problemas y por contra hay otro modelo que desde la izquierda desde la social democracia está basado en la democracia en los mecanismos de redistribución automática del sistema en el control público de la economía en los mecanismos de solidaridad pública

de la ciudadanía ante la vida y la enfermedad y ese modelo tiene en cuenta que la economía por mucho que nos lo hayan repetido no es algo patrimonio de los empresarios o de los banqueros y mucho menos es algo que surge por generación espontánea la economía afecta a todo el mundo

por lo tanto la economía yo lo suelo decir es un bien público

de forma conjunta por la ciudadanía y las instituciones públicas para ponerla al servicio de la sociedad y no como pasa ahora que la sociedad está al servicio de una economía que está arruinando su vida otra cosa es que haya diferentes agentes con diferentes funciones hacen falta entidades financieras sí hacen falta empresarios sí

hacen falta políticas públicas que garanticen un desarrollo

de progreso para todos y para todas una economía sin políticas públicas sin estrategias de futuro que coordine a todos los agentes y fuerzas se convierte

y saqueados dejando una sociedad depauperada mientras los vencedores se alejan con el botín a otro campo de batalla yo quiero políticas

porque su ausencia sabemos a dónde nos lleva a la situación en la que estamos

que defendemos los socialistas y que esta tarde se plasmarán en nuestras resoluciones primero control de las entidades financieras ya sé que me van a decir algunos que este tema supera el ámbito competencial de este parlamento

absolutamente necesario contar con otro modelo financiero

nos ha traído la ruina y el beneficio desorbitado de grupos de presión organizados bueno pues es necesario compartimentar estrictamente los mercados financieros y las actividades de los actores financieros y prohibir a los bancos especular porque esa no es su función debemos limitar las transacciones

y poner tasas que graven con contundencia los movimientos especulativos no es de recibo que para abrir una pequeña tienda se tenga que tener en cuenta

de normas de cargas de todo tipo y que en quince días un fondo

empresas y ciudadanos sin ningún control segundo garantizar el acceso al crédito a todos los proyectos empresariales viables especialmente a nuevas iniciativas de emprendimiento mientras no logremos que las entidades financieras cumplan de forma eficaz y a costo razonable su función porque esta sí que es

la administración pública debe adoptar medidas para poner un fondo a disposición de los diferentes proyectos empresariales instamos por ello al gobierno vasco a mejorar y a aumentar los fondos para avales y créditos a las empresas vascas asimismo instamos al gobierno vasco a crear un fondo de inversión para el fomento del emprendimiento en euskadi con el objetivo de financiar los nuevos proyectos

los de base tecnológica un fondo compartido y participado por las diferentes administraciones entidades financieras locales y por el propio banco europeo de inversiones junto

que a cambio tendría beneficios fiscales tercero la creación de un entorno jurídico eficaz y seguro fomentando la homogeneidad

y la eficiencia de los sistemas burocráticos las iniciativas empresariales no deben tener problemas ajenos a su propia actividad por ello instamos al gobierno vasco a unificar las condiciones administrativas

únicos simples y rápidos los requisitos necesarios tanto para poner en marcha una nueva actividad una nueva empresa como para las relaciones de las empresas con la administración y para el acceso a los planes de ayudas cuarto fomentar

y no los intereses exclusivos del capital las relaciones laborales deben tener un sistema transparente y previsible no se pueden cambiar cada dos años creando

la garantía del proyecto empresarial y la justa distribución de cargas y beneficios entre los diferentes agentes la desregularización

y el empeoramiento de las condiciones laborales de trabajadores

pone en riesgo el futuro de la propia empresa al facilitar los cierres de actividad y el movimiento

por ello entendemos que es absolutamente necesaria la participación leal y conjunta de los trabajadores y empresarios en la defensa del proyecto empresarial es necesaria una mayor flexibilidad y adecuación de todos a las necesidades de producción de las empresas que puede afectar a horarios calendarios y sistemas de organización pero deben de ser adoptados conjunta y en una economía como la vasca en la que una parte muy importante de trabajadores y trabajadoras pertenecen a microempresas los convenios colectivos son

imprescindibles y nuestra obligación tiene que ser facilitarlos y respetarlos por eso planteamos crear foros de encuentro mesas de diálogo social tanto en el ámbito público como en el privado para buscar mejorar las relaciones laborales en euskadi por eso planteamos asimismo la supresión

así como el acceso a todo tipo de ayudas a las empresas que estén fuera de los convenios sectoriales como medida para reforzar estos convenios

planteamos la derogación de la reforma laboral impuesta por el gobierno de españa porque precisamente es contraria a todos estos planteamientos

elaboración de un plan estratégico para la modernización y el crecimiento de la economía vasca la administración debe poner en marcha políticas públicas en el ámbito económico

que estén basadas en los siguientes criterios la colaboración entre administración y empresas

fomentando la agrupación empresarial y la colaboración entre ellas para que puedan ser más competitivas continuar con la puesta en marcha de proyectos empresariales estratégicos

especialmente en los ámbitos de las nuevas tecnologías y los nuevos nichos de mercado planes de ayuda para la inversión y modernización de las empresas permitiendo el acceso a nuevas tecnologías que las hagan más competitivas planes específicos para incrustar conocimiento en esas empresas

las de pequeño tamaño que tienen más difícil el acceso a procurarse ingenieros doctores personal altamente cualificado la puesta en marcha de un plan euskadi internacionalización reforzando las estructuras públicas existentes y fomentando los consorcios y las uniones de empresas para que puedan incorporarse a nuevos mercados en el extranjero el impulso a la innovación y a la investigación en las empresas vascas siguiendo con el esfuerzo en el incremento

sustancial la relación entre el mundo empresarial y el universitario sexto impulso a la sociedad del conocimiento no podemos ser competitivos si no incorporamos conocimiento a la economía los buenos profesionales son nuestra mejor inversión

mantener y mejorar el sistema de educación en euskadi crear entornos de investigación atractivos para que sirvan

buscar una mayor colaboración de las empresas y los centros de fp creación de planes para que jóvenes vascos con formación adquieran experiencia en empresas de alto nivel en el extranjero e impulsar planes de programas mixtos de formación

desempleados séptimo un modelo económico con mayor y mejor distribución de la riqueza es necesario recuperar los mecanismos de redistribución automática

el modelo fiscal es una parte del modelo económico y se nos ha olvidado que una de sus funciones fundamentales es la redistribución lo decía antes en las últimas décadas

es una burda mentira decir que una mayor presión fiscal por sí misma ahoga a la economía es radicalmente falso una fiscalidad justa y suficiente

y garantiza el sostenimiento de políticas públicas de crecimiento de hecho los socialistas proponemos que los recursos que se obtienen de la actividad económica

en políticas públicas de crecimiento por eso proponemos que lo que se recaude de la revisión de bonificaciones y exenciones del impuesto de sociedades

íntegramente en políticas de impulso a crecimiento económico y proponemos que el cincuenta por ciento al menos de lo recaudado en la lucha contra el fraude fiscal se dedique a planes de empleo además la fiscalidad debe ser una herramienta eficaz para poner coto

de los salarios de los directivos y altos cargos de las empresas no hay nada que justifique que una persona gane cien veces más que otra que trabaja en la misma empresa y podemos poner coto a esto a través de la fiscalidad octavo

la administración pública no es solo burocracia y servicios públicos es una parte sustancial también de la economía el gasto público juega un importante papel en el modelo económico

que supla las deficiencias del sector privado son la garantía de una economía fuerte y debemos de ser capaces de introducir conceptos como productividad eficiencia competitividad y las medidas que los desarrollen en nuestras administraciones como garantía de sostenibilidad

ciudadano noveno políticas públicas de empleo

el elemento que crea la barrera de mayor desigualdad social en las sociedades modernas por eso los socialistas defendemos acciones directas en la creación de empleo

por ello proponemos planes públicos para la contratación de desempleados un plan conjunto del gobierno vasco las diputaciones y los ayuntamientos

tienen el acceso al mercado de trabajo y queremos hacer hincapié en cuatro grupos los jóvenes que están soportando una tasa de desempleo dos veces mayor que el conjunto de la sociedad

los está convirtiendo en trabajadores obsoletos sin ningún futuro las mujeres las mujeres de todas las edades y las familias que tienen a todos sus miembros en paro tenemos que poner en marcha medidas que palien de la única manera posible que es con un empleo

y ante esto no cabe medias tintas la administración tiene que convertirse

y décimo políticas públicas para el estímulo de la economía y el empleo y con ello me estoy refiriendo

inversiones en proyectos estratégicos que son generadores de empleo en sí mismos

que mejoran la competitividad y la productividad de la economía vasca y me refiero también a planes renove en sectores que necesitan del estimulo público para sostener sus actividades y que tan buenos resultados han dado en el pasado se me ha acabado el tiempo estas son algunas de las propuestas

ampliadas y complementadas en las resoluciones que presentaremos esta tarde lo he dicho antes no se trata solo

de las consecuencias de la crisis se trata de cambiar el modelo económico que nos arruina se trata de denunciar las mentiras reiteradas del neoliberalismo porque detrás de la mayoría de las medidas que se están impulsando en europa no hay razones económicas hay razones ideológicas un fanatismo

que nos está conduciendo a una espiral de pobreza y que pone en riesgo la cohesión social los socialistas queremos decir basta a esta locura la economía debe volver al ámbito del control ciudadano debe asumir su función social los que apuestan porque la economía no debe tener ningún límite ningún control lo que están haciendo es vestir de aparente raciocinio económico los intereses

las ovejas para los socialistas la economía es una tarea colectiva que debe generar progreso y bienestar para todos y todas creemos en el libre mercado sí pero en un mercado que no esté

por los tiburones especuladores y para eso hace falta control público para garantizar precisamente igualdad de oportunidades a todos los agentes económicos los socialistas creemos en la iniciativa y en el esfuerzo sí pero nos negamos a apoyar un modelo económico de depredadores y apostamos por la economía real

para los socialistas la defensa de nuestra economía no es solo una línea roja es la línea roja que no estamos dispuestos a cruzar porque es la garantía

del progreso colectivo y de nuestro modelo social no aceptamos el dogma de la austeridad expansiva que nos lleva al suicidio colectivo no

que recortar recortar y recortar como proponen algunos sea un programa político es nuestra ruina por eso nuestro objetivo aquí hoy es que demos una respuesta colectiva diferente

para sacar a euskadi y a la sociedad vasca adelante eskerrik asko eskerrik asko lópez jauna gainerako taldeen txanda mistoa upyd taldearen

buenos días a todas y a todos buenos días señores consejeros señor lehendakari el grupo

un interesante y desde luego necesario debate sobre medidas de crecimiento económico y lucha

efectivamente la situación de crisis económica en la que nos encontramos y el crecimiento del desempleo son sin duda el problema fundamental que tenemos a día de hoy

sobre el que más esfuerzos debemos realizar los representantes de los ciudadanos estamos hablando de crisis económica crecimiento del desempleo recortes sociales y amenazas de más recortes sociales incremento de la pobreza incremento de la desigualdad dramas personales y familiares eres despidos desahucios desesperación

crecientes creo que los representantes políticos debemos siempre tener como objetivo primordial garantizar y proteger el bienestar de los ciudadanos y por tanto

nuestra principal labor debe ser tratar de impulsar las medidas necesarias para superar esta situación cuanto antes y superar esta situación no es cuadrar las cuentas o cumplir el objetivo de déficit sobre todo luchar contra la pobreza la exclusión y la desigualdad social luchar contra el paro atender como merecen a los que menos tienen e implementar

y poder crear empleo estable y de calidad es decir todas las políticas deben tener ese objetivo

algunas cosas podemos hacer también desde aquí y esperamos que este pleno monográfico sirva al menos para que podamos debatir y aprobar algunas de ellas supongo que hoy el gobierno nos anunciará algún plan de empleo y algún plan de financiación para pymes que al fin y al cabo es al gobierno al que corresponde

en nuestra opinión este asunto a euskadi le llegó la crisis económica más tarde que al resto de españa pero llegó y arrecia actualmente con fuerza esto que euskadi no es una isla y que por lo tanto lo que ocurre fuera nos afecta y no solo la crisis global nos está afectando con virulencia sino que las decisiones políticas y económicas que se toman en la unión europea o que se toman en españa nos afectan para bien o para mal si se toman

nos beneficiarán si se toman desde esos ámbitos medidas económicas o decisiones políticas equivocadas nos perjudicarán lo cual no quiere en absoluto decir

sino que lo que debemos hacer es involucrarnos y participar en las soluciones que en otros ámbitos se tomen de manera solidaria y pensando siempre en el interés

en el interés general de esta o salimos todos juntos o no salimos en ese sentido las decisiones en materia económica tomadas por parte del gobierno central en los últimos tiempos nos están perjudicando gravemente la culpa de ello de españa sino de este gobierno de españa que es cosa distinta y de las decisiones que está tomando este gobierno en concreto de españa así la decisión de impulsar recortes sociales sobre recortes sociales

reducir el sueldo a los funcionarios congelar las pensiones impulsar recortes en educación sanidad o dependencia o reducir la ayuda

no son solo decisiones injustas sino que son decisiones y medidas claramente contraproducentes para remontar esta situación diabólica las políticas de austeridad son un verdadero disparate nosotros abogamos por la austeridad selectiva es decir reducir lo innecesario reducir lo superfluo

importante salvaguardar el estado del bienestar y la cohesión social e incentivar la actividad económica ayudar a nuestras empresas en todo lo que sea posible sabiendo en todo caso que los poderes públicos pueden poner las condiciones

en última instancia las empresas los empresarios los emprendedores quienes terminan creando riqueza

mención especial merece la última reforma laboral aprobada por el actual gobierno de españa una reforma claramente injusta sin otro objetivo que facilitar

meses sufriendo del mercado de trabajo me referiré más adelante pero en nuestra opinión necesitamos una reforma laboral que corrija las últimas reformas laborales que se han aprobado en españa los datos son terribles el paro en euskadi sigue creciendo

a un paso del récord histórico de los ciento ochenta y ocho mil trescientos marcado en enero de mil novecientos ochenta y ocho casi cien mil desempleados en bizkaia casi treinta mil desempleados en álava

desempleados en gipuzkoa tenemos una tasa de desempleo del

el aumento mensual del paro en euskadi fue del uno coma cincuenta y cinco por ciento

por tanto el paro crece en euskadi a mayor ritmo que en el conjunto de españa tenemos

respecto a febrero de dos mil doce lo cual se traduce en un incremento del once coma siete por ciento

del seis coma noventa y seis por ciento en euskadi hay registradas noventa mil trescientos setenta y siete paradas frente a

por tramos de edad el mayor incremento en términos relativos fue en el de los menores de veinticinco años que suman ya un ocho por ciento del total un verdadero social además las mujeres soportan una mayor precariedad con un cincuenta por ciento de sus contratos a tiempo parcial

un diecinueve por ciento menos que en enero y un catorce por ciento menos que un año antes de ellos únicamente tres mil setecientos ocho es decir el ocho coma cincuenta y seis por ciento tuvieron carácter

el año dos mil doce además fue el año con más despidos en casi dos décadas la destrucción de empleo vía ere se disparó el año pasado alcanzó

desde mil novecientos noventa y seis además las previsiones no son muy buenas según todas las fuentes seguirá creciendo el paro en dos mil trece otro dato curioso a tener en cuenta en nuestra opinión euskadi ha creado

empleos públicos en la crisis y ha destruido ciento cuarenta y cinco mil privados datos

un mejor comportamiento que otros años y que se mantiene la tendencia de ralentización del ritmo de aumento del paro registrado no pueden engañarnos la situación dramática obviamente es el gobierno vasco quien debería liderar quien debe liderar la salida de la crisis y plantear las medidas necesarias para ello sabiendo en todo caso que no vivimos en una isla hasta la fecha hemos tenido un gobierno parsimonioso

y pasivo un gobierno que no se ha puesto el mono de trabajo para lograr objetivos de creación de empleo y lucha contra la crisis económica efectivamente

y acciones concretas no basta con protestar no podemos mantenernos de brazos cruzados este gobierno no puede mantenerse de brazos cruzados necesita plantear medidas implementar planes aprobar acciones concretas para salir de esta situación

nosotros como ya hemos reiterado en varias ocasiones y respecto a los presupuestos vascos como un instrumento para salir de esta situación nos opondremos

con recortes sociales pero también nos opondremos a unos presupuestos que no sirvan para incentivar la actividad económica y crear empleo estable y de calidad en este sentido de lo que conocemos hasta ahora nos llama negativamente la atención

un treinta y tres por ciento y los recortes que se plantean en el departamento de empleo y políticas sociales un veinticuatro por ciento e incluso los recortes que se plantean

finalmente no sea así pues la investigación y el desarrollo son la base de nuestro futuro en este mismo sentido los recortes impulsados por el gobierno de españa

y una losa para nuestro bienestar presente y futuro el gobierno vasco no debería seguir ese camino por tanto

y luchar contra la crisis ya anda tarde el gobierno vasco porque a día de hoy no ha planteado prácticamente o sin prácticamente ninguna

el estado del bienestar y el gasto social el lehendakari hablaba recientemente de apretar los dientes y mirar hacia delante sin buscar la gloria no es mala actitud pero esto debe acompañarse con medidas y planes concretos medidas justas y efectivas medidas útiles para el conjunto de la sociedad no repetiré debates ya habidos pero para salir de la crisis y crear empleo necesitamos lógicamente recursos es indispensable una reforma integral del sistema fiscal vasco con dos objetivos prioritarios más y mejor contra el fraude fiscal e impulsar las medidas fiscales que sean necesarias para impulsar la actividad económica y el empleo y obviamente hacer de este sistema fiscal un sistema fiscal más justo y más progresivo lo cierto es que con la última reforma laboral

empeora por momentos en esto también el partido popular y el partido socialista obrero español se parecen bastante ambos reforman el mercado laboral para precarizarlo para abaratar y facilitar el despido en definitiva

en los últimos años y por eso digo que en este asunto el partido popular y el partido socialista obrero español se parecen bastante así gracias a esta

las empresas han venido haciendo un uso abundante de la posibilidad del despido y no solo por la recesión sino para sustituir a trabajadores fijos

se permite el despido por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa

o la disminución persistente en su nivel de ingresos o ventas entendiendo por persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos pocas empresas incumplen

no entraré en mayores análisis pero ni la limitación de contratos temporales ni el contrato para la formación ni el contrato por aprendizaje

son en nuestra opinión solución a la situación del desempleo en españa y en euskadi

comprobando el contrato único indefinido

que defiende upyd habría sido una solución mejor proporcionaría un marco estable a la contratación y haría innecesarias las costosas bonificaciones la última reforma acomete también cambios trascendentales en la negociación colectiva

se ha pasado de frenada el empresario puede gracias a ella imponer cambios en la jornada en la movilidad geográfica o incluso reducciones salariales con relativa facilidad es que estamos ante una reforma injusta que ha fracasado estrepitosamente y que no solo no ha creado empleo sino que ha facilitado su destrucción y ha reducido derechos sociales nosotros tenemos algunas propuestas sobre la materia como decía antes reforma del mercado del trabajo en profundidad

todos los nuevos contratos deberían ser indefinidos y los temporales suprimidos excepto para sustitución de bajas y empleos temporales verdaderamente

debería aumentar progresivamente en función de la antigüedad el nuevo modelo laboral permitiría a los nuevos trabajadores entrar en el mercado de trabajo como indefinidos con menor indemnización al principio hasta convertirse en indefinidos con una indemnización alta

bruscos esto aumentaría la protección del trabajador medio e incentivaría la formación dentro de la empresa habría que implantar

facilitando así el cambio voluntario de puesto de trabajo conservando el derecho a las indemnizaciones acumuladas desarrollar la contratación a tiempo parcial haciéndola atractiva y competitiva promover más racionales semejantes a los del resto de europa que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral incentivar en las empresas la instauración de sistemas de teletrabajo mejorar las políticas activas de empleo

para desempleados mejorar los servicios públicos de empleo exigir la estricta vigilancia de la política de prevención de riesgos laborales

la movilidad geográfica así como la reducción de trabas

entre comunidades autónomas apoyar las iniciativas que supongan ventajas fiscales para las familias eliminar los numerosos obstáculos y trámites injustificados que aún subsisten para la creación de empresas reduciendo sustancialmente las cargas administrativas que soportan y el tiempo de

que han de cambiar el modelo productivo sino que sobre todo proporcione las condiciones favorables para que los empresarios puedan hacerlo en lo que se refiere al contrata único indefinido que nosotros proponemos

según los estudios realizados por prestigiosos economistas no sería muy distinto

beneficiarían de una relación más estable y duradera con el trabajador lo que permitiría formarle y disponer de trabajadores de mayor calidad y más productivos

además necesitamos planes de empleo

un plan de financiación para nuestras empresas necesitamos impulsar la creación de nuevas empresas necesitamos fomentar las exportaciones

en los existentes desde luego necesitamos mejorar nuestro sistema educativo desde la primaria hasta la secundaria la formación profesional y la universidad

emprender reformular los programas existentes y actualizarlos internacionalizarse arriesgar apoyar la internacionalización de nuestras empresas

la internacionalización también de nuestros recursos humanos de nuestros estudiantes

en conclusión y para ir terminando para salir de la crisis es indispensable abandonar la senda de los recortes sociales por injustos

políticas para el crecimiento económico y destinar nuestros recursos a lo importante salvaguardar el estado del bienestar las políticas sociales la igualdad la sanidad la educación y la cohesión social necesitamos también y hay que decirlo también en este parlamento reformar el estado autonómico

e ineficiente necesitamos reformar el entramado institucional vasco y su sector público acabar con las duplicidades las ineficiencias y la desigualdad

necesitamos impulsar una reforma integral del sistema fiscal para hacerlo más justo y progresivo y para poder obtener recursos que sirvan para salvaguardar

económica dentro de esa reforma integral del sistema fiscal y con esos mismos objetivos necesitamos de manera prioritaria además luchar más y mejor contra el fraude fiscal y en concreto un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal que esperamos ciertamente que se ponga en marcha cuanto antes y que las competencias fiscales residan en el parlamento vasco los recursos

son escasos el consejero de hacienda nos lo recuerda prácticamente a todas horas

los recursos son escasos por lo tanto debemos marcarnos prioridades abandonar obras socialmente innecesarias o económicamente insostenibles

por las inversiones productivas y por infraestructuras que sirvan

e incentivar la actividad económica apostar por la investigación y el desarrollo ayudar a la internacionalización de nuestras empresas

internacional reindustrializar euskadi y apostar por sectores emergentes y de futuro el sector energético el de la automoción la robótica

necesitamos medidas de estímulo y financiación de la actividad productiva especialmente entre las pymes y con especial atención a los autónomos indispensables sin ningún tipo de dudas políticas públicas para mejorar la economía y garantizar el progreso la igualdad y el estado del bienestar no hay soluciones mágicas

no dependen de nosotros no dependen de este parlamento pero algunas cosas se pueden hacer y efectivamente esperamos que el debate de hoy sirva

gracias señora presidenta muy buenos días señorías el grupo

la celebración de este monográfico que ha coincidido en el tiempo con la conmemoración del ocho de marzo

estos días nos sirven fundamentalmente para que reflexionemos de forma especial sobre algún tema que en este caso es la situación de la mujer en nuestra sociedad

sobre la situación laboral de las mujeres en dicho informe se pone de manifiesto que no se ha avanzado nada en igualdad en los últimos siete años

cobra un veintiocho por ciento menos que el hombre si tiene estudios superiores los contratos a tiempo parcial

y cobran un cuarenta por ciento menos de pensión la mujer dedica cuatro coma cinco horas a las tareas del hogar

cifra similar a la de hace siete años esta es una fotografía vieja de la situación laboral de la mujer que lógicamente se ha visto agravada por la

y que nos obliga a tomar desde las instituciones medidas concretas dirigidas a erradicar estas diferencias estos son los datos que he planteado dejan a la vista

fotos no sirven para avanzar en igualdad real esperemos que el debate de hoy termine con la aprobación de propuestas concretas dirigidas a lograr la igualdad al menos esa es la intención con la que el grupo popular ha presentado una batería de propuestas en este sentido que esperamos puedan salir adelante como decía al comienzo de mi intervención el grupo socialista nos ha planteado este pleno monográfico

y leo textualmente los socialistas vascos entendemos que es necesario que el parlamento vasco en aras a dar una respuesta conjunta que permita adoptar

y en medidas que ayuden de forma directa a los parados actuales celebre su debate

no podía entender que plantearan este monográfico sinceramente teniendo en cuenta que ustedes han abandonado el gobierno apenas hace

y con una estrategia vasca de empleo dos mil once dos mil catorce aprobada por su gobierno que fue debatida en este parlamento hace menos de un año

en el que se incorporaron propuestas de resolución de los diferentes grupos lo que nos lleva a la conclusión de que usted considera un fracaso su plan de empleo

su continuidad sino que se plantea que este pleno en este día de hoy lo sustituya por una serie de medidas que ustedes no incorporaron al plan

porque aunque sabían que eran necesarias se las guardaron hasta este momento esto no tiene lógica salvo que como ya intuíamos

quisieran aprovechar esta mañana para una vez más echar en cara a las diputaciones una supuesta falta de colaboración en la reforma fiscal y a la que según parece entender de su intervención también achacan su incapacidad para gestionar las competencias que el gobierno vasco tiene en materia

y por otra parte y esto era de manual nos ha hecho una escenificación señor lópez de la oposición del partido socialista a la reforma laboral impulsada por el gobierno de españa me gustaría comenzar con lo referente a la reforma laboral

de denostar eso sí sin plantear una alternativa real en su intervención más allá de la demagogia a la que ya nos tienen acostumbrados

señorías el desempleo es con toda seguridad el principal problema que afecta a la economía española

únicamente desde una perspectiva económica sino que como es lógico la falta de recursos acaba convirtiéndose en un problema social debido a que la falta de

a la exclusión social en este sentido la coyuntura económica también afecta como no puede ser de otra manera a nuestra comunidad autónoma euskadi no es una burbuja no vivimos de forma aislada y por tanto nos vemos afectados por un contexto económico que vivimos y a pesar de que en el país vasco los efectos de la crisis se notaron con mayor retraso

también son muy negativas en marzo de dos mil nueve existían en la comunidad autónoma vasca ciento veintiuno mil personas en situación de desempleo y según los últimos datos

lamentablemente nos encontramos muy cerca del récord histórico para esta comunidad situado en los ciento ochenta y ocho mil parados alcanzados en el año mil novecientos ochenta y ocho el paro existente en nuestro país

que se está dilatando en exceso en el tiempo pero que hunde sus raíces en causas de carácter estructural

excesivamente rígido aquejado de determinados vicios que eran necesarios atajar y corregir la crisis económica que atraviesa españa desde el año dos mil ocho

laboral de nuestro país la gravedad de la crisis actual no tiene parangón y no tiene precedentes ya que nuestro país ha destruido más empleo y a un mayor ritmo que el resto de las principales economías de nuestro entorno más inmediato esta destrucción de empleo ha sido más intensa en ciertos colectivos especialmente los jóvenes

en busca de un futuro que aquí no se les ofrece la incertidumbre a la hora de entrar al mercado laboral los reducidos sueldos iniciales y la situación económica provocada por los años de una política económica

desequilibrada y basada en una filosofía política de incontinencia del gasto público ha dado como resultado que los jóvenes con mayor talento decidan embarcarse

el desempleo de larga duración también es otro de los problemas laborales heredados como lo demuestra

que la duración media es muy superior a la media de los países más desarrollados la crisis económica ha puesto en evidencia

de nuestro país los problemas de nuestro mercado laboral lejos de ser coyunturales apuntaban antes de la entrada en vigor de la reforma laboral a un carácter claramente estructural afectando los fundamentos mismos de nuestro modelo socio laboral y requerían de una reforma

que pese a los cambios normativos experimentados en los últimos años se antojaba imprescindible además de ser reclamada por los principales organismos

bien intencionado fueron reformas todas ellas fallidas la gravedad de la situación económica cuya máxima expresión ha sido la destrucción de empleo

inmediata y con carácter urgente que proporcionara a los operadores económicos y laborales un horizonte de mayor seguridad jurídica

en el que desenvolverse con certeza para recuperar la senda de la creación de empleo la reforma laboral aprobada por el gobierno es un texto completo y equilibrado que contiene medidas incisivas y de aplicación inmediata con el objeto de establecer un marco claro

eficaz de las relaciones laborales y que en primer lugar ralentice y frene la destrucción de empleo para posteriormente servir como instrumento básico para la creación de puestos de trabajo disponíamos por tanto de un modelo de relaciones laborales que necesitaba de una reforma estructural

la movilidad y lo hiciera mucho más ágil y dinámico la reforma apuesta claramente por el equilibrio en la regulación de nuestras relaciones laborales

y externa entre la regulación de la contratación indefinida y la temporal o entre la movilidad interna de la empresa y la de los mecanismos extensivos del contrato

por tanto en el principio de flexiseguridad todos los aquí presentes somos conscientes de la importancia que tiene la formación profesional

la reforma realiza una apuesta muy decidida por una formación profesional que favorezca el aprendizaje permanente de los trabajadores

el pleno desarrollo de sus capacidades personales el trabajo a tiempo parcial señorías sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país a pesar de las diversas reformas normativas dirigidas a reducir la alta temporalidad lo cierto es que a nivel de esta modalidad contractual debe ser disminuido

va en esa dirección el tejido productivo nacional está formado principalmente por pequeñas y medianas empresas que no superan los cincuenta trabajadores que en el país vasco conocemos bien era necesario proporcionar los instrumentos normativos que faciliten la contratación de trabajadores por parte de este tipo de empresas que representan más del noventa y cinco por ciento del tejido empresarial con este objetivo se creó la nueva modalidad de contratación por tiempo indefinido con el ánimo de impulsar este tipo de contratación es evidente que la

anteriormente responde a una situación sin precedentes por ello se hace imprescindible si queremos mantener nuestro tejido productivo

a la realidad la reforma establece mecanismos fundamentales para que la empresa pueda adaptarse a su propia situación y que el despido sea el último recurso empleado por la propia empresa la reducción de los costes o la flexibilidad de los horarios laborales

realidad y suponen una herramienta fundamental y alternativa al cierre empresarial se trata por tanto de medidas que persiguen adaptar los salarios

y a la competitividad empresarial en paralelo a la situación económica que nos está tocando vivir por tanto y como conclusión de este apartado hay que poner en relieve que la crisis económica iniciada en dos mil ocho ha convertido a españa

en el país con más desempleo de la unión europea la rapidez e intensidad de la destrucción de empleo en españa se debe fundamentalmente como ya he dicho a la rigidez del mercado laboral español como ha sido

tanto por organismos internacionales como por la unión europea las medidas adoptadas desde el inicio de la crisis para reformar el mercado laboral español se han revelado insuficientes e ineficaces para conseguir crear empleo

euro y la deuda pública española y las recomendaciones de la unión europea

del mercado laboral español que permitan iniciar la recuperación

española se requería la adopción urgente de esas medidas para generar la confianza necesaria para que los agentes creadores de empleo realicen nuevas contrataciones

empleo con esta reforma laboral se pretende crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo

y los inversores por tanto la urgencia de su aprobación se fundamentó

concretos que el gobierno de españa clarificó señor lópez lo que he querido es hablar de realidades

eso es lo que he querido poner de manifiesto porque usted se ha dedicado durante veinte minutos

y durante veinte minutos nos ha querido vender algo que no se lo puede comprar nadie como que la situación de crisis económica que estamos viviendo viene después de no sé cuántos años de gobiernos neoliberales usted sabe que no es así

quienes han estado gobernando han sido los socialistas y que precisamente es ahora el partido popular

por voluntad de los españoles de esta situación y tratar de cambiar todo eso que usted ha estado denunciando toda esa desregularización del sistema financiero

bajada continua de la presión fiscal globalización de la economía

y que había que combatirlo es lo que ustedes durante todos estos años que han estado gobernando no solo en españa sino también en europa es lo que han ido instalando

que es el modelo que ahora el partido popular está tratando de cambiar y de modificar para poder poner las bases para la recuperación económica

y si bien es cierto que el año dos mil doce ha sido un ejercicio negativo en materia de empleo porque fundamentalmente lo que yo creo que en esta vida hay que ser realista para poder tomar las decisiones adecuadas y no es menos cierto que comienzan a existir signos de ralentización en materia de destrucción de empleo

pero es evidente que esa ralentización debe ser el primer paso para iniciar la senda del crecimiento

pero también es cierto que todas las previsiones indican ya sean realizadas por organismos internacionales como nacionales

de la recesión económica y desde este grupo reconociendo nuevamente las dificultades que estamos atravesando también queremos expresar que existen signos de ralentización de la destrucción de empleo

es que con el nuevo marco de relaciones laborales aprobado por el gobierno ya no será necesario un crecimiento de nuestra economía

para crear empleo sino que con una tasa de crecimiento del cero coma cinco por ciento del producto interior bruto será suficiente para comenzar a crear puestos de trabajo esto señor lópez en cuanto a cosas concretas

de la reforma laboral algo concreto con lo que ustedes partido socialista no están de acuerdo usted no me ha hablado de cosas concretas me ha hablado de cosas demagógicas

pero volvamos a euskadi y en concreto al ámbito de nuestras competencias como decía anteriormente el nueve de marzo del año dos mil doce

dos mil catorce realmente era dos mil doce dos mil catorce pero por aquello de justificar ese año que no sabemos lo que estuvieron haciendo pues

dos mil catorce la citada estrategia pivotaba sobre tres objetivos fundamentales que cito de forma literal tal y como lo expreso la anterior consejera el primero perseguía el aumento de la actividad económica de la población para aumentar el número de trabajadores el segundo pretendía la mejora del empleo estable y la calidad coherente con el principio del derecho al trabajo

venga acompañado de una dimensión cualitativa de calidad y estabilidad el tercero la mejora de la productividad y de la calidad

sobre seis ejes primero la mejora de la competitividad empresarial

tercero el fomento del empleo de los jóvenes cuarto el fortalecimiento de la cohesión social y territorial quinto la mejora de los servicios y recursos para el empleo garantizar el control y la evaluación de las directrices

su estrategia y sus políticas de empleo han sido un fracaso porque fíjese ha dado la sensación de que usted llegaba no se sabe de la nada

como quien es nuevo y no asume que usted ha estado al frente del gobierno vasco durante tres años

contaba con este instrumento que es el plan estratégico de empleo

con una ley de emprendedores que si la hubiera puesta en marcha

usted ha planteado aquí como novedades en cuanto a la creación de fondos y demás

por tanto podemos hablar señor lópez del fracaso de sus políticas de empleo porque la realidad no engaña y según los datos de lanbide al cierre del ejercicio pasado

en situación de desempleo y en materia de género los datos siguen poniendo de manifiesto que las políticas

y aplicadas por el gobierno vasco no han dado los resultados esperados si tenemos en cuenta que en la misma fecha citada anteriormente había

mujeres desempleadas en la comunidad autónoma vasca

no le moleste a la consejera actual el que los pueda dar

empresas causados según sus propias palabras y de este asunto

no por la reforma laboral sino por la ausencia de crédito esa es la realidad que estamos viviendo en la presentación de esta estrategia hoy por hoy vigente se colocaba como punto central de la creación de empleo

oído un segundo nombrar a lanbide ese instrumento con el que los anteriores gobiernos

en la creación de empleo y en la lucha contra el desempleo en euskadi

necesitaría un pleno monográfico a parte señor lópez

porque la gestión que han llevado a cabo su gobierno después de lograr semejante instrumento con

que acompañaban la transferencia y solo se han dedicado a fijar el número de personas que tenían que trabajar dentro de lanbide

colocarlas primero a dedo y luego con una decisión de este parlamento tuvieron que hacerlo a través de un concurso público pero que a día de hoy según nosotros tenemos los datos

una rpt mire señor lópez la situación es dramática la situación requiere de realismo no de palabras huecas no de discursos que hoy usted estaba lanzando yo creo que más hacia madrid o no se sabe hacia donde que lo que

tenemos que hacer uso de nuestras competencias y dar soluciones en la medida de las competencias con las que cuenta euskadi a la situación de desempleo que estamos

comienzo estamos en una situación sin precedentes que requiere de medidas excepcionales

las medidas del gobierno de españa pero ha aplicado un conjunto de reformas estructurales de profundo calado dirigidas

la reforma laboral las sucesivas reformas financieras dirigidas a tratar de sanear las entidades financieras con el ánimo de que el crédito vuelva

y a las pymes esas son las principales porque toda esa situación de desregularización a la que usted

en su intervención esa situación que ustedes permitieron durante años en los años que estuvieron gobernando

y ahora usted coincide con nosotros en que fueron un error y que ese error

y eso es lo que está tratando de hacer el gobierno de mariano rajoy con sus reformas y esa es la senda que debe emprender también de forma inmediata

y sin más dilaciones el gobierno vasco actual porque mire

es verdad que ha sido el señor lópez el que ha iniciado este debate el que lo ha propuesto y que por tanto es inevitable que haya dedicado gran parte de mi intervención a sus palabras pero creo

no sería positivo ni estaríamos construyendo nada positivo si hoy solo viniéramos a hacer una crítica a lo que el partido socialista de euskadi no ha sido capaz de hacer

en euskadi debemos de mirar hacia delante y por tanto situarnos en la situación en la que estamos ahora que es con un nuevo gobierno del que todavía

los nombramientos de la estructura de su gobierno pero nada más y por tanto el grupo popular ha presentado unas cien propuestas dirigidas a diferentes sectores a la creación de empleo y a fomentar el empleo de aquellos sectores más desfavorecidas

que esperamos formen parte de lo que hoy nos gustaría que se pudiera aprobar y que fuera el compromiso de este gobierno traer

que tenga un reflejo claro de los problemas y de los colectivos que más están sufriendo esta situación de desempleo

señor consejero que cuanto antes traiga ese plan ese va a ser el objetivo fundamental del grupo popular en el día de hoy porque creemos que los ciudadanos están buscando soluciones prácticas soluciones reales más allá de discursos vacíos

por tanto vamos a exigir que este gobierno traiga cuanto antes ese plan para que lo podamos debatir y cuanto antes sea un instrumento

al servicio de lo que yo estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos que es la creación de empleo fundamentalmente de jóvenes y de mujeres

creemos que en el día de hoy hemos visto cómo se puede plantear en una situación complicada un discurso demagógico irresponsable en el que no se asume

y no queremos seguir mirando para atrás queremos mirar al futuro

está dispuesto a arrimar el hombro para poner en marcha aquellas propuestas aquellas iniciativas que realmente creen empleo con lealtad pero también con exigencia porque estamos viendo a este gobierno demasiado despistado

de que este gobierno nos plantee propuestas iniciativas que tengan un reflejo además presupuestario para que puedan llevarse a cabo

intentando aportar lo que ya está siendo una realidad en el gobierno de españa con iniciativas concretas e impulsar instrumentos que también han sido

puestos en marcha también por el partido popular como es la ley de emprendedores tenemos instrumentos que deben ser aprovechados

porque son los que realmente crean empleo muchísimas gracias

berresten dugu el trabajo es más que empleo es un concepto más amplio que el empleo incluye el empleo remunerado y el no remunerado incluido el trabajo doméstico y familiar es necesario ya

gero eta pobreagoak hoy es el empleo o la creación de empleo lo que nos ha traído a este debate el empleo desde nuestro punto de vista desde nuestro punto de partida el empleo

es la base para lograr el reparto de la riqueza y junto al reparto del empleo la política fiscal la política presupuestaria y la política social son elementos imprescindibles para conseguir una sociedad más justa y equitativa zerga politikaz badirudi

los distintos gobiernos siguen seguís como una correa de transmisión lo impuesto en madrid y madrid sigue a pies juntillas los intereses de los mercados capitalistas

colectivo de las personas por lo tanto otro ejemplo de hipocresía cuando se pone o ponéis en el centro de vuestra política a las personas cómo lo vais hacer si acatáis lo impuesto por los mercados que ignoran

administrazioa publikoa herri administrazioa si entramos al apartado del empleo en la administración pública nuestra preocupación y enojo se acentúa con creces no pensamos que es de recibo

por el consejero de empleo y políticas sociales o por el portavoz del gobierno en los últimos días

y falta de respeto hacia las trabajadoras y trabajadores

supondrá solo trabajar un poco más que es asumible o que

sustitutos sustitutas lo que pasa es lo que para ellos significa trabajar un poco más para muchas personas de empleos públicos inestables

al paro a más paro qué credibilidad tiene un gobierno cuando frivolizan estos términos y opta por destruir empleos es imposible defender

menos puestos de trabajo el gobierno ha decidido por decreto

y va en contra del logro social de las treinta y cinco horas además quiero recordar que esa ley tuvo el apoyo del partido nacionalista vasco

a las crecientes necesidades de este país siendo sumisos a lo que dicta y regulando las condiciones laborales por decreto y con esos decretos se debilita el sector público con el único objetivo de favorecer al sector

ezarritako murrizketa gordinei muzin eginez la administración debe ser generadora de empleo de calidad horregatik murrizketa politikak

repartir el trabajo tanto el remunerado como el no remunerado partiendo de la igualdad de oportunidades

y mujeres reducir la jornada laboral tanto para repartir el empleo

la vida laboral y extralaboral las jornadas reducidas las jornadas parciales y la conciliación no pueden seguir siendo una cosa de mujeres nos concierne a todas y a todos impulsar una red pública de servicios sociales que atienda

no autónomas y necesidades básicas de todas las personas asumiendo las tareas del cuidado que hoy están en manos de las mujeres prioritariamente implementar políticas eficaces

profesional poner en marcha un fondo estructural de inversión y creación de empleo equilibrar racionalmente los salarios para acabar con la desigualdad existente a igual trabajo igual salario acabar con la discriminación según

o el origen salario mínimo interprofesional superior al umbral de la pobreza situándolo

euros crear y fortalecer un sistema de pensiones público propio que responda también a la realidad y necesidades de las mujeres que han estado toda su vida o parte de su vida trabajando de manera no remunerada realizando trabajo reproductivo

recuperar la edad de jubilación a los sesenta y cinco años y del contrato de relevo a los sesenta años crear empleos de larga duración mediante el fortalecimiento del tejido productivo vasco fomentar la diversificación productiva producir bienes y servicios socialmente útiles mejorar la cualificación profesional aumentar la inversión productiva penalizar los movimientos especulativos fomentar el empleo verde fortalecer

para hacer aflorar la economía sumergida lana eta aberastasuna banatzea ere ezinbestekoa da

en este día ocho de marzo en el que se celebra el día internacional de las mujeres pasamos al tema que nos ocupa el pleno monográfico de empleo

lo que voy a hacer es exponer nuestra postura y nuestras ideas para intentar combatir

segunda parte responderé al resto de grupos

como partido humanista que somos las personas todas las personas son el eje que centran todas nuestras políticos y en ese sentido queremos una sociedad

dignamente entendemos el empleo como un factor fundamental para la participación

estamos convencidos del efecto integrador que tiene el empleo su importancia para luchar contra la exclusión social y la pobreza continuo con el discurso del lehendakari en lo referente al empleo

económica mi gobierno va a plantear la puesta en marcha del plan de choque por el empleo un plan que pueda ofrecer resultados en un corto plazo sobre cuatro áreas básicas de actuación que son

un programa específico de impulso al autoempleo fomento de la formación y el empleo juvenil dinamización del empleo en el sector de la rehabilitación de vivienda

de ahí tanto que nuestro programa electoral como el discurso de investidura del lehendakari tal y como me he referido señalan claramente como eje primero de la legislatura el empleo

señaló como el primero de sus compromisos de legislaturas el desarrollo de un

y para conseguir crear empleo entendemos que es necesario e imprescindible reactivar la economía a nuestro entender son actividades complementarias en dicho pleno de investidura respecto a la reactivación económica

un compromiso con el futuro de la empresa vasca que en el escenario de un mercado global está vinculado con la apuesta por la innovación y la internacionalización de un tejido económico más competitivo y abierto al mundo ahora pasaremos a mencionar los aspectos más importantes relacionados con el empleo

en la segunda parte de esta primera intervención de nuestro grupo respecto a estos principios que creemos que son imprescindibles tratar hoy

y mantenimiento del empleo un empleo de calidad son los principales retos que hemos asumido para esta legislatura la reactivación económica la recuperación del crecimiento

y lo importante en definitiva lo primero horregatik gure taldeak

osatu ahal izateko la creación y mejora de empleo en euskadi debe acompañarse de la consolidación de un sistema vasco de relaciones laborales que facilite el equilibrio entre los intereses de trabajadores y empresas un sistema que integre de modo sostenible la flexibilidad laboral que requiere la empresa la seguridad laboral de quienes trabajan y la protección social

entre los agentes sociales debe de constituir el eje de las relaciones laborales en euskadi además

como vía de creación de empleo y bienestar se deberán desarrollar políticas públicas que fomenten la cultura emprendedora en el conjunto de la sociedad vasca

a la juventud y el autoempleo y que favorezcan la puesta en marcha de nuevas iniciativas y proyectos empresariales estratégicos asimismo

exige políticas públicas que favorezcan positivamente la integración en el mercado de trabajo vasco de las personas y los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral

queremos poner en valor la labor de las empresas de inserción que han desarrollado un papel fundamental en los últimos años y son

en este campo mención específica merecen también los centros especiales de empleo que vienen trabajando desde hace años para la integración de las personas con discapacidad

finantzaketa babesteko berariazko plana es necesario un programa específico de apoyo a la financiación del capital circulante de autónomos autónomas y pymes destinado a evitar su estrangulación financiera además son necesarias iniciativas específicas

para reducir y para financiar los proyectos de inversión productiva entendemos también

otra fórmula a impulsar en coordinación con las diputaciones forales que son las competentes

con el pleno monográfico sobre la fiscalidad es aprovechar el examen profundo que se quiere hacer sobre esta cuestión para mejorar la fiscalidad de este colectivo mediante el establecimiento de un marco fiscal de apoyo

con mayor facilidad y holgura a sus obligaciones tributarias y para que dediquen parte de sus beneficios a la creación de empleo

gazteen enplegu plana hemos dicho y reiteramos es un factor fundamental para la participación integración e inserción plena en la sociedad por lo cual conseguir la empleabilidad de nuestra juventud es una prioridad de primera necesidad es vital dedicar esfuerzos y recursos a apoyar y favorecer el empleo de la juventud

son esenciales políticas que favorezcan el autoempleo y emprendimiento juvenil programas de primera experiencia laboral y perfeccionamiento profesional para el empleo

berriz ere hezkuntza eta ekonomiaren garapena eta lehiakortasuna sailekin elkarlanean el cuarto eje que creemos debe ser tratado en profundidad

debe tener un apartado específico dedicado a la formación para el empleo el aumento de la cualificación y capacitación profesional de la población activa

permanente de las políticas activas de empleo la inversión en formación es inversión de futuro y la principal garantía de empleabilidad de las personas trabajadoras

firme por el aprendizaje permanente durante toda la vida laboral los indicadores relativos a la proporción de personas ocupadas que reciben formación continua en la empresa

y permanecen muy alejada de los países nórdicos creemos que mejorando el funcionamiento de lanbide incentivar la puesta en marcha de programas de aprendizaje permanente y recualificación ocupacional de la población activa en euskadi para ello es necesaria la implicación de las empresas centros de formación profesional universidades y otros agentes privados en el diseño y desarrollo de los programas y cursos formativos orain dela gutxi legebiltzarrak honi buruzko legea tramitatzen hasteko adostasuna eman zuen

basada en el conocimiento en el aprendizaje permanente y en la investigación

la creación y el mantenimiento del empleo han de ser compatibles con el mantenimiento de los derechos de los trabajadores y la protección social con igualdad de oportunidades con la inversión en ciudadanía el quinto eje sobre el que debe versar el plan de empleo que esperamos es el fomento del emprendimiento que ha de sustentarse en un plan integral

además de tener capacidad de trabajo posean visión de oportunidad y sean capaces de asumir riesgos y comprometer su patrimonio y su tiempo persiguiendo una idea

un gran número de personas con este impulso y es por ello que euzko abertzaleak entiende que el fomento de la actividad cultura y educación emprendedoras es de vital importancia para generar actividad económica empleo y progreso se deben apoyar desde las administraciones públicas programas que fomenten y desarrollen las capacidades emprendedoras en los distintos niveles educativos desde los primeros niveles hasta la formación profesional

es muy importante generar un alto nivel de sensibilización en la sociedad vasca en favor del espíritu emprendedor y el apoyo a las personas emprendedoras destacando el papel que juega la creación de riqueza y empleo a través del emprendimiento en una sociedad próspera y solidaria

se debe apoyar y ayudar a la creación de empresas que generen nuevos servicios y bienes que mejoren el bienestar de la población y que generen actividad económica contribuyendo

es necesario reforzar el apoyo a proyectos de nuevas empresas innovadoras de base tecnológica que son fuente de conocimiento especialización inteligente y empleo de calidad se ha de hacer una apuesta clara por nuevos sectores que nazcan con una fuerte cultura

que precisa del concurso de nuevas empresas y sectores intensivos en conocimiento la apuesta para contribuir a la creación de empleo debe ser apoyar de forma decidida por sectores de futuro para la economía vasca

de generar proyectos con capacidad de atraer personas investigadoras de la comunidad científica internacional y crear verdaderos polos de conocimiento con autentica

creemos que la mayoría de la cámara es sensible y está a favor de fomentar el emprendimiento como fuente de creación de empleo para conseguir que nuestra juventud tenga ofertas suficientemente atractivas para quedarse a trabajar en euskadi y por qué no para atraer nuevos talentos a nuestro país esta afirmación

tratadas recientemente en esta cámara y aprobadas con amplio consenso

euzko abertzaleak piensa que el ámbito de la vivienda que ha sufrido las consecuencias de la crisis de forma notable también es un sector a impulsar pero centrado más

que en la construcción de las mismas es un sector que ha generado empleo y que pensamos puede seguir generándolo en el futuro hay mucho que hacer

de comunidades de propietarios y de ámbitos degradados en nuestros municipios

con la accesibilidad así como con edificios energéticamente más eficientes y amables con el medio ambiente o que necesitan mejoras para su habitabilidad

creemos que existe un abanico importante de actuaciones a desarrollar a la rehabilitación y reforma de viviendas que además de generar empleo son una garantía de futuro al conseguir edificios más respetuosos con el medio ambiente

mejoran el bienestar de las personas más vulnerables como pueden ser nuestros mayores y personas con discapacidad también es importante

que se han quedado obsoletos y degradados no cumpliendo los estándares mínimos de habitabilidad aquí también tenemos un nicho importante en el que trabajar junto a los ayuntamientos

y competitiva a continuación

conjuntamente para generar empleo en euskadi queremos hacer una breve mención a lanbide la economía social y las relaciones laborales realidades

tal y como dijo el consejero de empleo y políticas sociales la tramitación de la rgi

la labor de lanbide por ello entendemos que se ha de aliviar al ente de las labores meramente administrativas no tiene sentido que personas jubiladas por ejemplo

cobrar los complementos que les corresponden porque de esa forma lanbide no se puede dedicar a su labor fundamental que no es otra que aumentar la empleabilidad

dando para ello una orientación formación e intermediación laboral lo más personalizada posible a fin de conseguir la empleabilidad de los usuarios

las políticas activas de empleo que se gestionan por medio de lanbide son un conjunto de programas y medidas de orientación al empleo y formación para mejorar las posibilidades de acceso al mercado laboral por lo tanto incluye la intermediación y colocación en el mercado laboral

la contratación la formación continua y profesional por lo que hay que descargar a lanbide de las labores meramente administrativas para que se pueda dedicar a conseguir la empleabilidad de los usuarios y usuarias respecto a la economía social estamos convencidos que las empresas de economía social han hecho una apuesta fuerte

a pesar de la crisis económica de hecho están respondiendo mejor a la misma por ello creemos que se han de impulsar programas de sensibilización ciudadana en esta materia específicamente en el ámbito educativo fomentando la formación del profesorado

con la educación para el consumo responsable el emprendimiento social y solidario las finanzas éticas

es importante apoyar la creación y consolidación de estructuras asociativas de las empresas de la economía social mediante programas específicos

se han de impulsar la innovación y el emprendimiento también en estas empresas creando los instrumentos que faciliten el acceso a la financiación

continuaremos apoyando al movimiento cooperativo para que pueda seguir avanzando deberán potenciar las funciones del consejo superior de cooperativas y de la representación social e institucional del sector de economía social en este sentido ayer mismo se aprobó una proposición de ley en este parlamento instándole al gobierno a que realice una comunicación

iniciativa aprobada con amplio acuerdo de la cámara puesto que euskadi es especialmente sensible al mundo cooperativo y las empresas de economía social que han tenido nuestro apoyo euskadi tiene una interesante tradición de empresas de economía social que reiteramos han demostrado ser una garantía de mantenimiento del empleo

erronka estrategikoei el modelo de relaciones laborales debe fundamentarse en el diálogo permanente entre los agentes sociales resulta necesaria una gran concertación social entre gobiernos sindicatos empresarios y sociedad civil de lograr acuerdos que beneficien a la sociedad en su conjunto buscando la confluencia de intereses y no la confrontación permanente en resumen

es la reactivación económica la recuperación del crecimiento y el empleo y para ello es vital la acción decisión voluntad ingenio y colaboración de todas las partes empresas trabajadores y trabajadoras sindicatos diputaciones ayuntamientos agentes económicos y sociales diferentes partidos políticos por último tenemos claro que para poner en marcha los tan necesarios planes

que van necesariamente unidos a nuestro entender hace falta financiación y por ello creemos imprescindible llegar también a acuerdos entre todas las fuerzas políticas

las acciones aquí contempladas para impulsar repito las tan necesarias reactivación económica y generación de empleo eskerrik asko